hace dos semanas tuvimos en este parlamento un debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres

la penalización que sufrimos las mujeres cuando somos madres zalantzarik gabe seme alabak zaintzea eta lana harmonizatzea

así sabemos que las administraciones públicas están adoptando medidas en este sentido para lograr un doble objetivo primero promover la conciliación de la vida laboral y familiar y segundo fomentar una mayor igualdad de género entre estas medidas están los permisos parentales y sobre esto señor consejero le queremos

aquí asimismo hace una semana en su comparecencia parlamentaria para presentar el plan de innovación de gobernanza e innovación pública dos mil veinte le escuché que una de las medidas concretas que incluirá el anteproyecto de ley de empleo público vasca

que hay que hacer algo para revertir esta situación para adoptar medidas que de alguna manera están sugeridas ya incluso formuladas

específico plan de la administración general y de los organismos autónomos que el ejecutivo aprobó la pasada legislatura en relación con esta materia de un sistema de permisos de parentalidad que cumpla los requisitos

consideran indispensables para que pueda alcanzar los objetivos que se le suponen tres requisitos que son primero que tengan exactamente la misma duración

de su género en segundo lugar que tengan carácter intransferible que no sean transferibles entre las personas integrantes de la pareja y en tercer lugar que sean

es un planteamiento ambicioso es un planteamiento muy exigente para la administración pública lo asumimos y somos conscientes de ellos de hecho un sistema de este tipo no está todavía

para verlo vigente hay que mirar al norte a los países más avanzados en esta materia pero solo con un sistema de este tipo la administración pública hará posible avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres y sobre todo también fomentar la corresponsabilidad entre

en el cuidado de los menores así como asegurar el derecho de los menores a recibir un cuidado y una atención de las dos personas integrantes de la pareja la medida está incorporada efectivamente como ha señalado usted en el borrador anteproyecto de ley de empleo público que próximamente dentro de unos meses se remitirá a la cámara a efectos de que en fin los integrantes de la cámara puedan debatirlo

que constituye un gran paso adelante y es bueno que

con el máximo rango en una norma con rango de ley y que haya sido objeto previamente de un debate

modélica para el sector privado por parte de la representación de la ciudadanía eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bigarren puntua

egun on guztioi solemos utilizar el adjetivo de faraónica para referirnos a ciertas obras que se considera que son desmesuradas

satisfacer las necesidades de promoción de propaganda o de autobombo de quien las encarga que a responder a las necesidades reales de la ciudadanía

que pasa desapercibido que quizás no es conocido por el gran público y es que las obras en el antiguo egipto se hacían por parte de trabajadores libres en nuestro imaginario colectivo está la imagen de los esclavos construyendo pirámides bajo el látigo hasta la muerte pero eso no es así la egiptología más moderna nos dice que eran trabajadores

bien pagados bien alimentados y bien abastecidos y a mí me surge una duda y es que teniendo en cuenta estas circunstancias de los constructores de las pirámides y teniendo en cuenta que ha pasado mucho tiempo efectivamente casi o más de cuatro mil años pero teniendo en cuenta los cambios históricos

en mejores circunstancias laborales que el estadio de san mamés la pirámide

el estadio de anoeta y claro eso a mí me parece bastante preocupante que el faraón fuera mejor patrón

arau gardenak dira bermeak eskaintzen dituztenak todos los contratos públicos se llevan a cabo en el marco de la normativa comunitaria y estatal

las condiciones de contratación vienen reguladas por la ley tres barra dos mil once de contratos del sector público los criterios de adjudicación están determinados por ley concretamente en los contratos de obras en los que las condiciones técnicas las determina el proyecto si solo hay un criterio de adjudicación

lehendakari si ustedes aplican la ley y sigue habiendo

la precariedad así describe la principal sindicato de este país las condiciones en las que se está desarrollando la obra pública más importante de la historia

el tren de alta velocidad es el ejemplo de la precariedad absoluta una selva sin leyes cuyo único objetivo es su ejecución y la inspección mira hacia otro lado cosas similares nos dicen los sindicatos sobre la incineradora de zubieta la autovía de descarga

yo estoy convencido que si tuviéramos a gente trabajando en nuestras casas

nos escandalizaríamos y no lo permitiríamos eta hori da eskatzen dizuguna

usted sabe perfectamente que está hablando de una ley básica del estado de una ley básica del estado sabe perfectamente de lo que está hablando

en la contratación publica y que los pliegos de cláusulas administrativas en la contratación del gobierno vasco establecen condiciones con carácter obligatorio para garantizar

seguridad social seguridad y salud laboral y condiciones laborales mínimas estas condiciones obligan a las empresas contratadas a cumplir un porcentaje de contratación laboral indefinida

son las cláusulas administrativas en la contratación del gobierno vasco berriro diot eusko jaurlaritzaren kontratazioek

es prueba concreta señor casanova del compromiso del gobierno con los derechos de todas las personas que trabajan para el sector público eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

egun on lehendakari jauna hace unos días el tribunal superior de justicia del país vasco confirmó aunque con menor cuantía las sanciones
impuestas a varias empresas de catering por pactar los precios de los

estas prácticas han supuesto un sobrecoste millónario para las familias y para la administración al mismo tiempo

abrir una comisión de investigación la semana pasada lehendakari jauna qué medidas tiene previsto tomar su gobierno concretamente en este caso

para que entre otros y principalmente las familias recuperen el dinero eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor martínez usted pregunta por el sobrecoste millónario

es falso que como usted dice se haya producido un sobrecoste millónario para las familias en realidad

se establecen de forma previa a la licitación del concurso y si se produce un déficit lo abona la administración en su integridad de hecho

no han cambiado en cinco años con el anterior contrato y con el actual las familias pagan lo mismo eskerrik asko

señor lehendakari estamos hablando de algo que todas las investigaciones se ha visto que se lleva dando durante

de doce años es una evidencia en esta cuestión que existen responsabilidades

asumidas quedó demostrado que existía un pacto ilegal entre siete empresas de catering que pactaron al alza los precios de los menús escolares y que esto ha provocado sobrecostes de cara a estas responsabilidades políticas y de hecho a la determinación de este año patrimonial lo importante

durante doce años no porque lo plantee yo es que el propio tribunal superior

he hablado antes reduce las sanciones impuestas a las empresas argumentando que una de las causas en este caso es la inacción del gobierno

si hay algo sangrante dentro de este caso es el daño

indeterminado pero importante en estos menús escolares porque como explicaba el señor becerra la semana pasada ya en su intervención

evaluable económicamente y que además es un daño individualizado y que los requisitos que exige

que han recibido estas familias y que el gobierno vasco no ha querido investigar

porque se dice que no ha habido reclamaciones claro cómo va a haber reclamaciones si no se sabe cuánto

y por eso no pueden hacer estas reclamaciones es una pescadilla que se muerde la cola de manera recurrente aunque la realidad

que existe un daño para las familias no quieren levantar esa alfombra

la que se va a ver que luego debajo está toda la porquería no están dispuestos a calcular el dinero tanto que las familias han pagado de más como que el gobierno ha pagado de más cifra que a buen seguro es millónaria la cifra que es millónaria

en el que todo parece que funciona bien en apariencia pero donde luego se ven las costuras en cuanto se indaga un poco pero ya

qué se va a hacer qué van a hacer ustedes para que estas familias que sí están afectadas que como he dicho antes han sufrido un daño comprobable y calculable recuperen su dinero

así lo avalan todos los informes jurídicos económicos y técnicos el año dos mil trece primero de la anterior legislatura y antes de finalizar

acometió la elaboración de unos pliegos más exigentes para la contratación del servicio de comidas escolares está claro que hemos adoptado medidas señor martínez y le reitero en cuanto a la afección económica a las familias es falso que como usted dice

un sobrecoste millónario para las familias en realidad insisto también las cuotas de comedor que abonan las familias se establecen de forma previa a la licitación del concurso le diré también que las familias no han perdido nada

el precio es el mismo cuatro coma sesenta euros muy inferior al coste real del servicio y además le diré también

alumnos cuentan con beca de comedor y no pagan nada el cuarenta y ocho por ciento el gobierno destina este año veintiséis millónes de euros a este fin

y es importante destacar que estas medidas se tomaron de forma previa a la resolución de la autoridad vasca de la competencia y las medidas adoptadas se han demostrado eficaces

y la resolución de fecha de tres de octubre del año dos mil diecisiete

ha garantizado aún más si cabe la concurrencia entre las posibles empresas licitadoras y ha mejorado el servicio a los centros y le leo la resolución

e instruidas por cuanto no ha quedado acreditada la existencia de indicios suficientes de infracción

sí gracias señora presidenta señora san josé conocemos perfectamente su determinación expresada en cada ocasión que ha tenido para tratar de evitar el fraude

relacionadas con las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras de nuestra comunidad autónoma al poco de acceder a dirigir al departamento de trabajo y justicia ustedes pusieron en funcionamiento un buzón antifraude laboral con el fin de complementar la labor de la inspección de trabajo y seguridad social

otro inconveniente este buzón estaba fundamentalmente pensado para servir a trabajadoras y trabajadores

que esta no existe nos pareció en su momento una buena iniciativa y creo que está recogiendo sus frutos no obstante nosotros pensamos que la herramienta básica

constituye esta un instrumento sumamente relevante para velar porque se cumpla la ley se puedan prevenir situaciones no deseadas y puedan sancionarse los casos en que se contravengan las normas por otra parte me parece muy interesante que hayan puesto en valor la labor de la inspección en euskadi

usted acompañada de otros cargos del departamento dieron cuenta de las actuaciones más destacadas de la inspección de trabajo y seguridad social el año pasado nos anunció que una de las prioridades que se habían marcado era la revisión de los contratos a tiempo parcial según usted misma nos comunicó

que justificadamente eran a tiempo parcial de los que debían ser indefinidos se ha logrado según los datos aportados por ustedes que casi dos mil

se hayan convertido y transformado en indefinidos es decir el trece por ciento de los contratos revisados

es este un dato significativo por lo que es más si lo comparamos con los convertidos en dos mil dieciséis que no llegaron a mil pero la inspección de trabajo y seguridad social actúa en otros ámbitos y con otras líneas de trabajo así es de resaltar que a lo largo del dos mil diecisiete se hayan logrado dos mil seiscientos ochenta y seis altas en la seguridad social

que hayan aflorado esos empleos sinceramente señora consejera cifras que demuestran la dedicación

otro aspecto destacable es la colaboración que se da entre la inspección de trabajo y el instituto vasco de la seguridad

para la prevención de la seguridad y salud en los centros de trabajo en la investigación y seguimiento de los accidentes de trabajo

apoyamos su posición más favorable a la prevención que a la sanción y es importante la cifra que ustedes nos aportaron de ocho millónes de euros

a expedientes liquidatorios que en su mayoría corresponden a fraudes en cuotas de la seguridad social en suma un gran valor que no cabe duda

y de sus prioridades para dos mil dieciocho muchas gracias eskerrik asko

voy a realizar la valoración que usted me propone y voy a aportar datos relevantes de la actuación de la inspección de trabajo y seguridad social y voy a darles cuenta de los objetivos de la misma y de los que nos hemos marcado para el año dos mil dieciocho

y me va a permitir señoría comenzar diciendo que la inspección de trabajo actúa por impulso de dos vectores

planificadas sobre las cuales establecen prioridades actuaciones que se dirigen tanto a la vertiente laboral como a la de prevención de riesgos laborales y por otro están las actuaciones denominadas rogadas que se derivan de las denuncias y de las peticiones de los órganos jurisdiccionales

gestoras de la seguridad social las denuncias las presentan las organizaciones sindicales o directamente los propios trabajadores y trabajadoras por lo tanto comprenderá usted la importancia que tiene

su puesta en común con la inspección además también es fundamental la colaboración

interinstitucional por eso cuando en dos mil diecisiete nos comprometimos a revisar primordialmente los contratos a tiempo parcial así como perseguir el fraude en la contratación temporal lo hicimos conscientes de que afectaban más a las mujeres porque nuestra finalidad eran incidir en algo de lo que ustedes señoría son plenamente conscientes y conocedores como es la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral

con más de doscientos cuarenta actuaciones añadidas a las que se han desarrollado en materia de contratos

afecta a las mujeres nuestro empeño es conseguir los objetivos propuestos para ello vamos a potenciar todas las campañas desarrolladas en dos mil diecisiete incidiremos en los planes de igualdad en las empresas vascas haciendo especial en los que exista brecha salarial para lograr esa meta propuesta por el departamento y la inspección durante dos mil dieciocho vamos a recalcar el trabajo sobre un sector muy feminizado como es el de la hostelería y más concretamente sobre el servicio de limpieza de habitaciones

que he comentado antes en la laboral analizando las posibles cesiones ilegales y las dobles escalas salariales y en la prevención de riesgos laborales dada la importante

animándoles tanto a ellos como a sus representantes sindicales que denuncien mediante las herramientas puestas a su disposición situaciones irregulares que detecten en la seguridad de que la inspección de trabajo actuará con sumo rigor

como bien decía señora sánchez nuestra prioridad no es la de sancionar pero sí el cumplimiento de la ley y desde luego actuar cuando esta

gracias señora presidenta señorías buenos días señor lehendakari ha causado inquietud la propuesta que presentó el grupo al que usted pertenece en la ponencia de autogobierno

es una propuesta lo digo de manera taxativa que no tiene encaje en nuestro ordenamiento legal a pesar de sus apariencias que desborda

la soberanía y aparece un nuevo sujeto que nace sin duda del derecho pretendido de autodeterminación invocan ustedes un principio muy curioso

la mayoría existente en el ámbito que ustedes determinen tiene una legitimidad que es igual a la de la ley por tanto e ignora como digo el principio de legalidad

que ya hemos recorrido esto se produce en un tiempo de estabilidad política que ha dado lugar a acuerdos importantes que ha permitido también fortalecer el autogobierno de manera decisiva

y se llegó también a acuerdos decisivos entre su gobierno y el gobierno de españa para liquidar problemas viejos como el del cupo

las reformas que necesita euskadi tiempo de satisfacción de los vascos con el estatuto hasta el setenta y siete por ciento y vivo contraste con lo que ocurre en cataluña en la medida en que mantenemos actitudes moderadas euskadi es vista como un modelo de convivencia

y no nacionalistas todo eso es lo que se pone en riesgo con propuestas como la que vimos el otro día mire su propuesta la propuesta de su grupo

hay una mayoría en esta cámara que la quiere impulsar si usted se echa al monte tiene mayoría y tiene apoyo mírelos hoy han venido muy pocos pero estos le dan la mayoría para ir al monte para recorrer ese camino es una mayoría distinta de la mayoría que proporciona estabilidad y que ha venido sosteniendo a su gobierno yo

pero aquellos de ustedes que jugaron antes con fuego se abrasaron y abrasaron también a la sociedad vasca a la que llevaron un tiempo de enfrentamiento yo le pregunto

porque todos tenemos mucho que perder la sociedad vasca

euskadi tiene mucho que perder pero ustedes también tienen mucho que perder que es lo que vienen construyendo en acuerdos transversales con otras fuerzas y con el entendimiento que han podido construir con nosotros seguramente hay gente que está deseando que aquí entremos en un conflicto

para tratar de pescar alguna ganancia pero nosotros no y estamos comprometidos con la estabilidad y con la mano tendida y por eso yo le pregunto adónde nos quiere llevar

a ningún sitio donde no queramos ir eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor alonso a dónde nos quiere llevar

y yo le diré que la adhesión al derecho de autodeterminación define una posición política democrática y fíjese que el año mil novecientos noventa este parlamento

aquel pronunciamiento de hace ya veintiocho años ni supuso ni supone factor de inestabilidad pero

vengamos a la actualidad usted consume interesadamente el derecho

un derecho que por cierto le diré que es un derecho positivo vinculado con los restantes derechos humanos y que además es reconocido por el tribunal de justicia internacional

que no es posible sin negociación con el estado y sin el cumplimiento de los compromisos con los tratados y con los pactos internacionales pero usted confunde el derecho

confunde autodeterminación con el principio democrático del derecho a decidir

con voluntad integral de todas las formaciones políticas con voluntad pactada como es lo que se plantea y hoy no se está planteando el derecho de autodeterminación señor alonso

esta es la esencia de un sistema que garantiza que todas las ideas son libres y se pueden defender desde la legalidad por vías pacificas y democráticas

y es la ruptura de este principio la que conduce a la inestabilidad la exclusión y la imposición unilateral los portazos

la ausencia de diálogo con voluntad de acuerdo la extralimitación en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco todo esto sí genera inestabilidad señor alonso

mire la verdad es que yo esperaba un discurso más anestésico por su parte no una encendida defensa del derecho de autodeterminación como la que ha hecho hoy aquí

independentistas nacionalistas las que usted quiera porque se lo garantiza el ordenamiento jurídico pero también tiene una responsabilidad como lehendakari no ser lehendakari de partes sino ser lehendakari de todos una sociedad

la responsabilidad de no meternos a todos en un conflicto esa es su responsabilidad y su responsabilidad es al menos es tan importante como el derecho de usted de pensar

en el gobierno sus portavoces en la ponencia de autogobierno

han garantizado la estabilidad del estado y ha ocurrido en legislaturas muy complicadas y con gobiernos de diferente signo y como contrapartida tan solo hemos pedido que el gobierno español asuma sus responsabilidades y cumpla la ley por ejemplo

y son otros los factores los que contribuyen a la inestabilidad política en españa y destacaré uno el déficit de cultura democrática el déficit

de alcanzar acuerdos para resolver la crisis del modelo territorial mire contamos con una ponencia sí y quiero creer que compartimos el objetivo de actualizar y profundizar en nuestro autogobierno

pero habrá habido formaciones que hayan entendido la necesidad de ajustarse a aquello que es abalado por una mayoría significativa de la sociedad vasca algunas formaciones como a la que pertenezco se han exigido realismo flexibilidad

desde el máximo consenso señor alonso y fíjese ayer el ochenta y ocho por ciento de esta cámara aprobó reivindicar la defensa del autogobierno como derecho la capacidad y la voluntad que históricamente tiene y manifiesta la ciudadanía vasca para que las decisiones que le afectan

ustedes votaron en contra y tuvieron la oportunidad de votar a favor el acuerdo interno es el que seamos capaces de alcanzar el que redundará

más y mejor autogobierno tenemos la oportunidad de alcanzar ese consenso también

ubera el gobierno no se va a precipitar en tomar

justo en un momento en el que el gobierno central el promotor el autor de ese conjunto de normas básicas que coartan el autogobierno vasco está planteando seriamente y de manera pública y explícita la revisión de la normativa básica en la materia y esto por razones sencillas de economía eficacia y eficiencia

estamos hablando de gestionar setenta mil empleados y empleadas públicas una reorganización de la jornada laboral

distribuidas en ámbitos de organización completamente distintos con funcionamientos y regímenes de radicalmente dispares supondría un esfuerzo organizativo que a lo mejor quedaría en agua de borrajas si dentro de un mes o mes y medio el gobierno central en una de estas del señor montoro se le ocurre modificar

obligaría a reorganizar todo de nuevo en un esfuerzo insisto organizativo

a los pronunciamientos de los tribunales no precipitarse en la adopción de decisiones

cuando el propio gobierno central está anunciando próximamente medidas que vayan a alterar por lo visto radicalmente el marco normativo básico vigente en esta materia

en la aplicación de este tipo de normas que aplicarlas supondría abordar un esfuerzo organizativo

por qué estamos de acuerdo o por qué nos parece positivo porque permitirá que la energía circule libremente sin fronteras entre los estados miembros eso hará que podamos compartir la generación renovable de todo el ámbito europeo

se pueda producir la disminución de precios para los consumidores tanto empresas como particulares y que además se puedan generar nuevos empleos en aquellas empresas que estén trabajando no solamente en el momento de la obra si no en todo lo que va a llevar como consecuencia además desde el punto de vista medioambiental bueno colabora en todo lo que se ha establecido como estrategia en el ámbito europeo

la colaboración quiero insistir en lo firmado en el pacto por el clima en cuanto a la generación de energías renovables y su utilización de forma masiva y en el que exista una política única y que europa hable

en este ámbito además va a permitir reconfigurar reconexionar o mejorar la conexión existente entre muchos países que se encuentran entre ellos la península ibérica en su conjunto como una isla va a permitir que eso

que exista un sistema estable y que esa interconexión nos facilite mejorar la situación que se ha establecido en europa de tener un quince por ciento para el dos mil treinta

pues se equivoca usted otra vez señora tapia usted razona y se lo he dicho ya como delegada del ministerio de fomento de españa

quién tiene problemas de interconexión euskadi tiene problemas de interconexión yo diría que no

el sesenta y cinco por ciento de la electricidad que consumimos es importada por interconexión y europa hablaba de un diez o un quince por ciento tenemos el cien por ciento de interconexión tenemos problemas nosotros o los problemas los tiene españa en interconexión vamos a ver si la semana pasada los de miranda

en alta velocidad no tenían que pasar por euskadi porque era de su interés pues coja ese mismo argumento y ahora aplíquelo a esto es muy fácil

o acaso me estoy equivocando y tenemos problemas de evacuación de toda esa energía renovable que producimos cuando resulta que no producimos ni un diez por ciento en renovable es que da un poco la risa si lo que se trata es

o de poner aquí a funcionar a tope las centrales térmicas de gas que están muertas de asco por caras baje y diga eso pero esto no porque no es verdad ninguna de las razones que se dan hay unas alegaciones al proyecto que yo quiero citar hoy aquí porque creo que dan en el clavo

el documento inicial carece de una justificación que ampare la inversión pública y la afección en el territorio y sobre las personas el proyecto apuesta por un modelo caduco y obsoleto

resulta contraiga las tendencias de fondo que apuestan por la generación descentralizada con consumo local y autoconsumo el sistema eléctrico

y se plantea un incremento de líneas de transporte para un consumo en descenso incomprensible fuera de los intereses privados de la propia empresa tan respetables como imposibles de confundir con el interés público en la necesidad social la potencia instalada

el máximo de la pontencia jamás consumida en definitiva su instalación

desde la lógica puramente venal de las grandes corporaciones que dominan el mercado por contra desde la lógica de los consumidores

resulta injustificado e inútil y dado su elevado coste una inaceptable despilfarro

beneficiaría al mercado energético al desarrollo de las energías renovables o a la seguridad de suministro y el regulador francés de la energía en junio del dieciséis decía que la interconexión existente está largamente infrautilizada en relación con la demanda así que puede concluirse que el proyecto contribuiría

siendo por tanto contraproducente para la transición energética etcétera etcétera etcétera

es que estas alegaciones vienen firmadas por la alcaldesa de gatika

al cien por ciento de acuerdo que está en su bancada y a la que yo creo que usted debe dirigirse en la réplica muchas gracias eskerrik asko otero jauna erantzuteko tapia andreea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea pues no me voy a referir a usted porque como es usted quien pregunta me voy a referir a usted

el que sabe lo que hay que hacer en este país en toda europa y en el mundo por lo visto

asesor mundial porque es lo que debería usted ser en cualquier caso le quiero recordar que esta infraestructura ni siquiera depende del ministerio de fomento entonces entérese un poquito porque esto depende del ministerio

que lleva el tema energético recuérdelo me habla usted de euskadi pero hace referencia a españa pero de todas maneras creo que la unión europea en su conjunto no debe estar tan equivocada cuando

hace una defensa de por qué hay que estar bien interconectado por qué hay que hacerlo y en qué condiciones se puede bajar la factura como consecuencia de una interconexión adecuada es innegable que aquella energía renovable que se esté produciendo yo estoy mire en lo único que estoy de acuerdo con usted es que

pero la podemos traer de otros lugares si estamos bien interconectados y entonces yo creo que se justifica

el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete en un pleno de este parlamento se aprobó por unanimidad una iniciativa a propuesta de nuestro grupo

la estrategia dos mil dieciocho dos mil veinte para el primer semestre del año entonces

por mes y medio por tanto decirle que el gobierno y en concreto este departamento que dirijo indicó

dos mil catorce dos mil dieciséis para el treinta y uno de diciembre y eso es lo que se acordó y lo que pactamos en ningún caso estaba prevista que fuera para el treinta de junio del dos mil diecisiete a mí no me consta que

dicho desde este departamento nos comprometimos también además a hacer esa estrategia vasca por la inmigración dos mil dieciocho dos mil veinte para el primer semestre del año dos mil dieciocho

y ese plan sí que va a estar para el treinta de junio la evaluación de la estrategia vasca por la inmigración se encuentra ya finalizada a falta de su maquetación y traducción y confío que la puedan tener a su disposición a lo largo de la semana que viene

así como el que está realizando también y trabajando en la estrategia ha mantenido contacto con más de ciento treinta y dos personas pertenecientes a instituciones organizaciones

y su propio grupo participó como bien sabe en una de esas reuniones de trabajo concretamente en la celebrada en su sede el pasado veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete

nos hubiera permitido obtener resultados antes pero al igual que en otras ocasiones

esa participación aún a costa de tardar más en su ejecución

de ese trabajo de evaluación y de ese trabajo de participación ha sido

o la renovación y dinamización del foro entre otros ejemplos el conjunto de agentes

una mejor integración de los diversos colectivos la participación activa del tercer sector y de los distintos agentes ha constituido un

y medio lo que es la presentación de esta evaluación y en relación

la previsión era la de disponer la evaluación para el treinta y uno de diciembre esta ha llegado ahora solo mes y medio más tarde debido a un retraso en las tareas de maquetación y de traducción y porque hemos primado
el proceso participativo para realizar una buena estrategia de inmigración eskerrik asko

de este parlamento y de los grupos que conformamos la oposición hacer control al gobierno y simplemente no se moleste porque le hagamos esta pregunta porque efectivamente

los temas cuando vengo efectivamente se habían comprometido para el treinta y uno de diciembre soy consciente del contenido de esta moción pero es que estamos a dieciséis de febrero y usted no ha tenido a bien dar una explicación antes pero es que aparte de eso

a finales del año dos mil dieciséis establecía el compromiso de presentar la evaluación en junio en su programa de gobierno concretamente el compromiso ciento cuarenta ustedes establecían el compromiso de actualizar la estrategia desde el parlamento se acuerda esto en el momento en el que ustedes se habían comprometido y se les dan seis meses más y aún así

en nuestra opinión esto no es un tema menor entendemos que en el tiempo social y político en el que nos encontramos la convivencia de la ciudadanía tiene que estar en un primer orden y

tres preocupaciones que a día de hoy seguimos manteniendo y por las cuales entendemos que es preciso la presentación

lo antes posible esas preocupaciones que manifestábamos era el riesgo a la superposición de planes porque existen planes como el de convivencia el de lucha con yihadismo o la trata

se pueden quedar cortos o atender solo parcialmente a la situación compartíamos también la preocupación por enfoques de distintos planes y el riesgo de que colisionen entre sí por eso urge la estrategia urge la claridad y urge la coordinación pero también manifestábamos el riesgo

en esta cámara y lo decíamos en octubre lo continuamos diciendo a día de hoy estas preocupaciones no se ven recogidas y no se observa el liderazgo que entendemos que es fundamental por su departamento consideramos que el hecho

como un veinte por ciento que sean percibidos los colectivos de origen

como el colectivo con el que menos empatías se tiene o incluso llegando al rechazo hacen que este tema tenga que estar en el centro de la agenda y no se tenga que dejar

en todas aquellas iniciativas que desde el departamento se entiendan como necesarias para contribuir a una mejor política de inmigración y convivencia pero no obstante no se

para no haber cumplido los plazos porque creo que aquí no hay otra escusa posible no están cumplidos y punto besterik ez mila esker

eskerrik asko señora guanche usted considera que no he cumplido

la propuesta que se aprobó en el parlamento con la unanimidad de esta cámara dijo que tenía que presentar antes de finalizar el año la última evaluación que es lo que no he hecho porque estamos a febrero lo que nosotros hemos primado es el trabajo colaborativo y el trabajo y la participación

sí que creo que estamos trabajando sí que creo que este gobierno tiene entre sus objetivos fundamentales el trabajar por la inmigración y la diversidad

los agentes con los que estamos trabajando además también le quiero decir que los datos de finales de año destacan

y de la gestión de la diversidad cultural nosotros hemos cumplido la moción
hemos cumplido perdón la pnl y para finales de junio tendrán la estrategia eskerrik asko

veintidós de marzo la consejera de empleo y políticas sociales anuncia medidas para mejorar la gestión y eficiencia de la renta de garantía de ingresos estas medidas son explicadas en la comisión celebrada el diez de abril

en el parlamento vasco y entre ellas nos hablaba la señora consejera de un sistema de identificación tanto de las personas usuarias como trabajadoras en diversas respuestas a preguntas formuladas por este grupo en relación a cuándo se iba a hacer efectiva esta medida anunciada por la señora consejera se nos ha respondido que estaba pendiente la implantación de esta medida tras la fase de selección técnica testado firma del convenio con izenpe

y realización de las pruebas piloto correspondientes queremos saber señora consejera con esta pregunta a ver si es criterio del gobierno vasco instalar implantar de forma

ya que usted anunció esta medida hace prácticamente un año eskerrik asko garrido

nuestro objetivo es implantar el sistema de identificación

nuestro objetivo también es la mejora de lanbide y de su gestión y afortunadamente las nuevas tecnologías digitales nos van a permitir avanzar positivamente en ese terreno

a lo largo de todo el año pasado hemos trabajado en un nuevo sistema de identificación electrónica

para conseguir procedimientos más ágiles y transparentes que den respuesta a las necesidades actuales de la sociedad la nueva tecnología digital es cada vez más utilizada en entidades financieras accesos a instituciones empresas instalaciones deportivas aeropuertos y hasta ahora

tenía un aspecto a mejorar en lo relativo a la identificación mediante distintos documentos cuando desde el departamento de empleo y políticas sociales hemos diseñado unas líneas de mejora del servicio de lanbide se ha planteado la incorporación

partiendo de la situación anterior la propuesta que se ha elaborado desde lanbide plantea la identificación mediante datos biométricos a todas las personas usuarias de lanbide este requisito exige una disposición habilitante y cumple con dos objetivos aportar una mejora en el uso de la identificación digital y mejorar el control para ello se ha trabajado con izenpe con el objetivo de acreditar la identidad de la ciudadanía en concreto se ha desarrollado un sistema

en los accesos a procedimientos telemáticos que sustituye a otros como son las tarjetas de coordenadas las claves de acceso es decir utilizando datos biométricos

que alcanza en una primera fase a diez oficinas de lanbide

va a garantizar en todo momento el respeto a las normas de gestión y uso y conservación de los ficheros donde se encuentra la información acorde al exigido por la ley orgánica de protección de datos cuestión muy relevante en este proyecto además el pasado mes de diciembre se inició mediante una orden de la consejera el procedimiento de elaboración de la norma por la que implanta la identificación electrónica mediante datos

implantación de una medida de estas características una medida de control que por cierto ustedes rechazaron la legislatura anterior quiero recordar el debate aquí planteado por el exalcalde javier maroto en relación a la implantación de este mecanismo

pretendíamos estigmatizar a los perceptores de la

la necesidad de establecer cambios en la normativa modificaciones

a reconocer como usted reconoció en la comparecencia sustanciada el pasado diez de abril la necesidad de mejorar la gestión de lanbide

preocupación y lo digo textualmente también pasaron de negar la necesidad de establecer una unidad de control específica en lanbide

implantar esa unidad de control tal y como venía defendiendo el partido popular desde hace bastante tiempo y plasmado en iniciativas concretas eso sí cuando usted dio las explicaciones oportunas en la comisión a la que acabo de hacer referencia sí

resaltó de forma significativa que esta iniciativa nada tenía que ver con la huella digital que el partido popular había planteado bueno conclusión el tiempo nos ha dado la razón y esos mecanismos que ustedes

pues parece ser que al final han ido reconociendo que en lanbide

en la comparecencia a la que he hecho referencia pero hechas estas referencias sí nos gustaría señora consejera que nos respondiera

a la pregunta concreta que le hemos formulado es decir es criterio del gobierno vasco proceder a la implantación de este mecanismo

creemos que esta cuestión se merece ya una respuesta teniendo en cuenta que llevan ustedes un año de legislatura que usted anunció esta medida

en el segundo trimestre del dos mil dieciocho que están realizando pruebas pilotos creemos

y aparte de medidas concretas como esta que también podamos ver más pronto que tarde una reforma integral de lanbide y la modificación del proyecto de
ley de la ley para la garantía de ingresos eskerrik asko garrido anderea

señora garrido el partido nacionalista vasco sí que rechazó y sigue rechazando la propuesta que el señor maroto presentó en esta cámara para identificar

y se focalizó el uso de esa identificación en un colectivo muy concreto es muy diferente a la propuesta que este gobierno ha planteado y que va a implantar en el

que significa una mejora en la gestión que desde lanbide vamos a realizar con todos los trabajadores con todos los usuarios de lanbide independientemente

respuesta a las necesidades que la nueva sociedad está demandando

las nuevas tecnologías en lo que son las organizaciones y las instituciones para mejorar y hacerlo de una forma mucho más ágil y transparente

no la vamos a utilizar únicamente para identificar sino también vamos a exigirla
para que se identifiquen las personas que en los cursos de formación de lanbide se presten eskerrik asko

eskerrik asko señora kortajarena galderagatik como sabe

y que ya hayan agotado todas las prestaciones o subsidios ordinarios además del plan prepara

el decreto ley uno barra dos mil once de febrero de dos mil once introdujo de forma coyuntural un programa temporal de seis meses de duración destinado a personas

su protección por desempleo estaba basado en unas acciones de mejora de la empleabilidad y de la percepción

y a las necesidades de esas personas se iba prorrogando de forma sucesiva tenía una serie de condiciones que la tasa de desempleo fuera superior al dieciocho por ciento

en agosto del diecisiete esa circunstancia no pasó y la tasa de desempleo fue inferior por lo cual no se pudo prorrogar automáticamente las comunidades autónomas tuvimos que dar por unanimidad

porque habían cambiado las circunstancias y además se produjo otra situación adicional que había una sentencia que daba la razón al gobierno vasco porque

había contravenía el orden constitucional ante esta situación y para asegurar la continuidad nosotros sí que dimos esa aprobación pero con una condición que se firmara un convenio bilateral

el gobierno de españa entre el ministerio de empleo y el gobierno vasco con dos objetivos o tres objetivos uno que fuera de forma excepcional y limitada en el tiempo y dos que también se tuvieran en cuenta que

unas prestaciones que desde el gobierno vasco se estaban ofertando a estas personas

presentaban en ese momento por tanto se realizó ese convenio

se recoge la compatibilidad y la complementariedad de nuestras ayudas se le dice al estado que es una medida excepcional y con una vigencia

y lo que le puedo decir en este momento es que nosotros también estamos preocupados estamos contactando con el ministerio de empleo con el objetivo de que nos informen de cuál es la situación en la que se encuentran de cara a no sabemos qué van hacer si van a unificar esas ayudas en una única ayuda en qué condiciones

sí que le estamos pidiendo al ministerio que nos informe y técnicamente los equipos de ambos gobiernos están trabajando con el objetivo de ver por dónde van a ir las nuevas ayudas que el ministerio dice que por los medios de comunicación nos hemos enterado
a establecer unas nuevas ayudas a partir del uno de mayo eskerrik asko artolazabal andrea kortajarena andrea zurea da hitza

y la verdad es que las políticas de madrid son políticas exiguas y totalmente inadecuadas para favorecer oportunidades de acceso al empleo para personas desempleadas y así son esas políticas unas políticas que no se ajustan para nada a nuestra realidad y que por tanto no responden a las necesidades de las personas con mayor vulnerabilidad y creo que

seguramente no va a merecer la pena y además ya sabe lo que dice el refrán que el que espera desespera pues creo que en este caso la evidencia que es ya casi científica

que necesita este país y la gente de este país eta ez gaude denbora pasatzeko

no sabemos cómo van a ser las nuevas prestaciones pero sí que le puedo decir que nosotros estamos trabajando por lo menos lo estamos intentando trasladas al ministerio y para ello hemos solicitado

responsabilidad cuáles son las medidas que podrían beneficiar a estas personas como le he dicho antes

de estas ayudas para los desempleados a larga duración nosotros sí que hemos conseguido algo que es muy importante y que hasta la fecha no estaba recogido que las ayudas que el estado estaba proporcionando a este colectivo en este momento pasado eran incompatibles con la renta de garantía de ingresos

convenio bilateral es que primero sean compatibles y segundo exista la posibilidad de complementar esas ayudas si las personas
necesitadas cumplen con los requisitos de nuestra renta de garantía de ingresos eskerrik asko

y por sus palabras señor consejero una puede entender que tienen un plan

al déficit ha dicho déficit de la seguridad social qué planteamiento tiene su gobierno en relación a la seguridad social sobre qué medidas trabaja su gobierno

zure hitzak berriak zirelako zure hitzartzeak nobedadeak zekartzalako porque señor consejero estamos hablando de una cuestión capital

a tener un estado de bienestar desarrollado que aspire a garantizar una vida digna a su ciudadanía

de toda su vida una cuestión que no se puede demorar más no se puede demorar por más tiempo

está pendiente desde hace treinta y ocho años una transferencia que todos y cada uno de los sucesivos gobiernos de madrid se han negado a transferir

representantes del partido popular y del psoe nos previenen utilizando para ello sin ningún miedo el espantajo nunca mejor dicho el espantajo

una competencia sobre la que los aparatos del estado con el tribunal constitucional a la cabeza no han dudado en incidir en incidir para limitarla y para ampliar la competencia del propio estado asumiendo competencias que no le corresponden en cierta manera a sustituir al legislador y yendo mucho más allá de lo que dice el tenor literal de la constitución y el tenor literal del estatuto

según ella para beneficiar a aquellos expulsados del mercado del trabajo en edad avanzada y con carreras largas de cotización

olvida voluntariamente que todas esas personas fueron expulsadas del mercado de trabajo gracias a la reforma del partido popular

han ganado poder adquisitivo en la última década y no se ruboriza lo dice y se queda tan ancha años de mucha crisis años de crisis en los que

en el parlamento que esas pensiones se han convertido en muchas casas

de crisis y hemos escuchado también por ejemplo a la señora villalobos

es presidenta de la comisión de seguimiento del pacto de toledo y ella dijo

es decir cobrando pensión que en activo es decir trabajando

desde mi humilde opinión totalmente irresponsable e incendiaria señor consejero

comparte la opinión y en esas andan en madrid señor consejero

mareando la perdiz a lo que nos tienen acostumbrados y los y las pensionistas han dicho basta y los y las pensionistas vascos y vascas han dicho basta

alto y claro que han perdido poder adquisitivo que quieren unas pensiones dignas que las viudas de este país después de años de trabajo

unas pensiones dignas y por supuesto por supuesto también existe la reivindicación de un sistema propio de pensiones porque ya ven lo que les está dando de sí el sistema estatal que los empobrece día

y a lo que usted me está requiriendo en su intervención de la forma más breve yo diría que clara posible le agradezco de antemano un poco también el piropo que me ha echado por la intervención del día cinco le agradezco que me dijera estas palabras que no suelen ser muy

tengo que decirle de antemano que evidentemente para el gobierno también

son muy importantes las pensiones y los pensionistas son muy importantes para este gobierno y desde luego va a hacer todo lo que tenga que hacer para defender sus intereses defenderemos los derechos de las pensiones y de los pensionistas pero también tenemos que ser conscientes de cuál es el marco legal en el que entramos para no generar falsas expectativas

yo creo que hay que actuar en este ámbito como en otros pero en este también especialmente con total responsabilidad con independencia de la inexactitud del entrecomillado que la justificación de su interpelación expone

la trasferencia estatutaria para buscarle una solución

no corresponde al gobierno vasco solventar el déficit de la seguridad social hasteko bada

en la que quise dejar claro que el déficit actual responde a una coyuntura pero que desde el comienzo el sistema español de seguridad social la contribución neta de los cotizantes vascos también es un hecho lo que el gobierno vasco desde siempre

a través del informe de actualización de transferencias pendientes

es el cumplimiento de las disposiciones estatutarias hoy en blanco desde hace casi cuarenta años es decir

que se transfiera la gestión del régimen económico de la seguridad social artículo dieciocho punto dos y que ello se hagan en el seno de la comisión mixta de transferencias a través de los convenios oportunos

y del respeto al principio de solidaridad al modelo

transitoria quinta nada más pero nada menos en resumen es imperiosamente necesario que el estado se siente y negocie el traspaso

para volcar sobre su contenido negociado bilateralmente todo el potencial estatutario que este gobierno ha de poder ejecutar aunque sea en el ámbito

de la seguridad social vigente en el estado modelo del que formamos parte pero cuya regulación solo compete al estado aunque tenga efectos en euskadi sabemos

sobre el propio régimen y que el modelo hoy por hoy no podemos cambiarlo pero

y este no lo es ha redundado en una gestión cercana provechosa responsable y que nos hace más autónomos cada día

eso es lo que deseamos en el tema de las pensiones señora pinedo lo que no quita para que desde el punto de vista estrictamente político

que entendemos también requiere una inmediata reconsideración así pues en resumen respecto a la transferencia y aunque se considera que el modelo de seguridad social

y serios problemas demográficos lo cierto es que negociar y conseguir la transferencia en los términos estatutarios actuales es algo irrenunciable para la comunidad autónoma de euskadi creo que estará de acuerdo con ello porque no en vano su grupo parlamentario ha presentado un proposición no de ley en este parlamento sobre la obligación de cumplir en su totalidad el estatuto de gernika lo cual

desean que como paso de futuro la gestión del régimen económico de la seguridad social quede en manos

sin embargo tanto si hay déficit o superávit actualmente en el marco territorial de la comunidad autónoma de euskadi ello no debe ser un elemento esencial a la hora de plantearse
negociar la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social eskerrik asko eskerrik asko

en una encuesta empresarios decían que no veían viable y le hablaban del déficit y usted contestó bueno yo creo que ahí está además estaba el señor bueno ahí está la transferencia que nos

solución y en ese momento la solución era al déficit señor consejero o por lo menos en esa frase

de comunicación porque usted me dice que hablemos con responsabilidad que no generemos falsas expectativas lo mismo le digo señor consejero

no estoy hablando de eso yo sé lo que yo quiero y estoy segura de que usted hoy aquí no ha dicho lo que realmente quiere porque habla en nombre de un gobierno

creo que ya se ha tenido que contener se ha tenido que contener señor consejero

es verdad el grupo eh bildu ha pedido que se cumpla el estatuto es más yo aquí en algún momento pedí expresamente que se hiciera la transferencia de la gestión económica de la seguridad social con todo lo que ello conlleva pero como lo dice el estatuto

con leyes de rango muy inferior al estatuto y a la propia constitución que no será la mía pero yo también

hoy usted me ha dejado caer al final del tema del grupo vasco pero es que no es solo el grupo vasco es que

entiendo me tiene que contestar como miembro del gobierno y yo lo voy a entender sin ningún problema en su propuesta en la comisión del nuevo estatus en la batzorde ha dicho

es que es tan vital que en las encuestas que se hacen a la población sobre la preocupación que tiene la ciudadanía sobre qué cuestiones valora bien qué cuestiones valora mal de los

que las pensiones en la valoración de los vascos no superan el cuatro coma tres

las pensiones les preocupan y no es que les preocupan les ocupan y encima les cabrean les cabrean mucho porque el gobierno español no está haciendo nada

porque no hay nada porque la presidenta de esa comisión de seguimiento del pacto de toledo la señora villalobos ya ha dicho lo que piensa y no es

pero evidentemente tampoco para los vascos y las vascas y a mí me preocupan hoy

y las vascas evidentemente y me preocupan mucho me preocupan mucho señor consejero y yo pensaba que usted había abierto una ventana en aquella conferencia de verdad se lo digo se lo digo sinceramente

como otras veces me ha pasado parece que fuera de extramuros de este parlamento usted abre ventanas que luego aquí se cierran eskerrik asko pinedo anderea azpiazu jauna zurea da hitza

no es mi intención defraudarle señora pinedo

reiterativo tan reiterativo como el cúmulo de iniciativas que a lo largo de las últimas legislaturas ha realizado el parlamento vasco con relación al sistema de pensiones y seguridad social en euskadi y en españa

como yo no quiero terminar esta intervención sin recordar con claridad la voluntad del gobierno

la gestión adecuada de la seguridad social y las pensiones por la que usted me interpela

de las políticas pasivas de empleo y de la gestión digna del régimen económico de la seguridad social en los términos estatutarios

a un parlamentario vasco en este mismo foro refiriéndose a la cuestión que nos ocupa entonces se dijo por boca del lehendakari y hoy lo mantengo que defendemos asumir la gestión

dentro de su carácter unitario y de respeto a principio de solidaridad todo ello mediante un convenio y añadía también quiero subrayar que la posición que defiendo

sino del propio parlamento vasco decía el lehendakari es una reivindicación institucional con soporte legal y respaldo ciudadano pleno y terminaba señalando que la seguridad social vasca es una garantía para las pensiones y autogobierno

por lo tanto en cualquier caso las instituciones vascas estamos dispuestas a asumir la gestión del régimen económico de la seguridad social así se pactó en el estatuto se refrendó por la ciudadanía y lo viene reclamando el parlamento vasco eso se dijo por parte del lehendakari yo creo que en el año dos mil quince y creo que tiene plena validez por otro lado y en relación con la polémica sobre la viabilidad económica

estructurales que pudieran presentar no cabe sino afirmar que las dificultades

de las que sufriría el sistema estatal en su conjunto pudiendo resultar incluso minimizadas las que

por la actual estructura de su mercado laboral hemos reivindicado siempre la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social lo hacíamos en tiempo de superávit y lo seguimos haciendo en este momento en el se han generado

de la gran recesión en cualquier caso los términos de la transferencia deben ser los de gestión y dentro del carácter unitario del sistema

de un convenio de conformidad con la disposición transitoria quinta de dicho estatuto mediante el que se deberán

se deberán completar asimismo los aspectos económicos de las prestaciones la colaboración entre ambas administraciones y la atribución

pero es que además de que lo que recoja el estatuto creemos que la asunción de la gestión es importante porque puede poner importantes mejoras

de todos los instrumentos de la protección social en euskadi y en el impulso de un sistema complementario de protección social y de previsión social

creo que queda bastante claro señor pinedo eskerrik asko eskerrik asko

buenos días señor consejero como usted sabe kutxabank tiene una cartera de participaciones industriales que en enero de dos mil doce estaba valorada

a día de hoy la valoración debe estar por la mitad aproximadamente más o menos y yo querría decirle en cumplimiento de las obligaciones que tiene su gobierno y de las competencias han trasladado ustedes a kutxabank alguna directriz respecto a cómo gestionar esa cartera de participaciones industriales y de cómo hacer la desinversión que le exige

zurea da hitza señor becerra dando una contestación directa a la pregunta que formula en su escrito debo señalar en primer lugar

ni en relación con la reducción de su cartera de participaciones ni en relación con ninguna otra cuestión cita usted en la formulación de su pregunta el artículo tres de la vigente ley de cajas de ahorro de la comunidad autónoma de euskadi aprobada el año dos mil doce

entre otras funciones la de supervisar la gestión inversora de las cajas y establecer directrices en materia de obra social para orientar está a las principales necesidades y prioridades sin embargo en la formulación que se pregunta parece olvidar el hecho cierto de que kutxabank no es una caja de ahorros

podría establecer directrices dirigidas a dicha entidad kutxabank es una entidad financiera es un banco creado a partir de tres cajas de ahorro vascas pero no es una caja de ahorros repito

y además no es el banco del gobierno vasco la regulación y supervisión le corresponde

básica del estado derivada en gran parte de los reglamentos de la unión europea por lo tanto las decisiones que pueda tomar kutxabank en relación a su cartera

de gobierno de dicha entidad de conformidad con los requisitos previstos en la legislación mercantil y financiera

de las tres cajas que son propietarias de kutxabank efectivamente quizás la pregunta no está formulada todo lo bien que debería pero usted sabe que

se ha planteado la posibilidad de que asuman parte de esas participaciones industriales de kutxabank y cómo se realice eso y cómo se haga tiene mucha importancia y tiene un papel el gobierno vasco que es necesario que reconozca usted aquí a día de hoy

qué cartera de participaciones industriales tiene cada una de las fundaciones qué planes tiene realmente kutxabank de desinversión

los ha mencionado en alguna aparición pública y ha sido preguntada la señora consejera tapia por este tema

y la realidad es que sigue siendo una información oculta opaca y la realidad es que el gobierno vasco sí tiene una competencia real en como ha leído usted supervisar la gestión inversora de las cajas las cajas son las propietarias de kutxabank a

con noticias como esta a finales de dos mil dieciséis donde dice fundación kutxa inicia la compra de participaciones industriales a kutxabank

la bbk dedicará cien millónes a comprar participaciones en empresas locales

su departamento el gobierno vasco tiene que controlar tiene que supervisar y que tienen una relación directa con la gestión de la cartera de participaciones industriales de kutxabank si su gobierno no tuviera ninguna competencia no entendería por qué el señor lehendakari en mayo de dos mil dieciséis en este titular aparece que sugiere que parte de las participadas de kutxabank acabarán en manos de las cajas si lo dice el señor urkullu es porque tiene que tener esa información y si tiene esa información y tiene esa competencia el señor urkullu lo suyo es que el gobierno efectivamente en cumplimiento de ese artículo tres haya trasladado a las cajas

que contribuyan a incrementar el desarrollo económico y social del país y eso significa arraigar esas participaciones industriales de empresas industriales vascas arraigarlas en las fundaciones bancarias entonces sí hay una competencia

y transparente y lo que no puede ser es que a día de hoy tengamos conocimiento de movimientos que hacen ustedes de compras de acciones de caf y de otras empresas

sin saber si eso está ordenado si eso está planificado si eso está hablado con kutxabank porque estamos hablando de miles de millónes de euros y posiblemente de miles de puestos de trabajo

en una situación de incertidumbre al respecto y por lo tanto me gustaría que de alguna manera asumieran esa responsabilidad y esa competencia que sí tienen gracias

y aparte de eso de una presión por parte de europa muy intensa

con kutxabank como con las fundaciones hay que tener un comportamiento exquisito desde el punto de vista de la intromisión de los bancos que desde luego este gobierno

pero como le decía kutxabank es una entidad financiera nacida de la integración de las tres cajas de ahorro vascas una integración que sin ayudas públicas ha resultado exitosa y sin que por otro lado se hayan resentido su compromiso su obra social como lo tenían las cajas pero no es menos cierto que kutxabank es la entidad financiera vasca

y un instrumento muy útil en todo caso para promover recursos en el mercado financiero a favor de nuestro tejido económico garantizando una financiación competitiva que ayude

y que a su vez le permita obtener los beneficios suficientes para garantizar la obra social de los accionistas que en este caso como le digo son las fundaciones bancarias bbk kutxa y vital y así por ejemplo kutxabank ha dado a conocer que en dos mil diecisiete

en operaciones de financiación de las empresas es un veintinueve por ciento más que en el ejercicio anterior

sigue participando y tiene vocación de permanencia junto con las diputaciones forales y el propio gobierno en otro fondo de participaciones como es ekarpen también como sabe

en las que colabora con las instituciones vascas el gobierno vasco seguirá

políticas en las que no me cabe la menor duda que contará con la colaboración entre otras entidades de kutxabank

siempre sin intromisiones y desde el respeto a la voluntad manifestada por sus órganos de gobierno eskerrik asko eskerrik asko

la nueva ley de aportaciones tenía que haber estado aprobada en el año dos mil once estamos en el año dos mil dieciocho yo no le voy a echar a usted la culpa porque evidentemente no está aquí desde el año dos mil once verdad pero hace siete años que tenía que estar

la primera excusa que se nos dijo es que había cuatro gobiernos distintos tres en las diputaciones forales distintos y uno en el gobierno vasco distinto luego la segunda excusa que se inventaron es que hacía falta llegar a un acuerdo con el cupo porque eso era fundamental y luego ya la tercera y definitiva fue que es que la ley municipal le obligaba a hacer un estudio bien la ley municipal

el gobierno hace un año se comprometió a que hace un año iba a estar ya ese proyecto hubo un acuerdo y bueno y después de todas estas vicisitudes yo ya sé que usted no es el responsable desde el año dos mil once

no tengamos esta ley de aportaciones pero sí es el responsable de la consejería de hacienda y economía y el responsable de que a esta cámara llegue alguna vez un proyecto de ley de aportaciones y por eso nuestra pregunta después de las múltiples declaraciones de todos ustedes

o la respuesta perdón es sí es una prioridad de este gobierno y así nos hemos manifestado este mismo martes

a tener terminado el informe general sobre competencias de los distintos niveles institucionales de euskadi

de mayo va con retraso sí pero también habíamos dicho que queríamos tener

y que eso era prioritario frente a tener una ley rápida que no dé

de instituciones la nueva ley de aportaciones será aprobada tal y como hemos adelantado ya en otras declaraciones en dos mil dieciocho

adoptaba el acuerdo por el que hemos aprobado el plan anual normativo correspondiente a este ejercicio en el que como puede comprobar

de aportaciones sé que a usted no se le escapa que esta no es una ley cualquiera que es una norma que requiere de un alto grado de consenso institucional y político al que

desde luego encantado porque nos hallamos ante un debate que concierne a todos los niveles institucionales del país

emateko ahalmena como decía hay que el complicado equilibrio entre la cobertura financiera de las diversas políticas públicas definiendo entre todos las prioridades de las mismas y las legítimas aspiraciones de

con la mejor financiación para sufragar los servicios que cada una de ellas presta a la ciudadanía vasca se trata por tanto de elaborar y aprobar una ley

una ley a la vez que tenga en cuenta las características socioeconómicas de cada territorio y proporciona asimismo un horizonte de certidumbre y estabilidad al conjunto de nuestro sistema institucional una tarea

pero que nuestro compromiso es que esté finalizada a finales de este año eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna damborenea jauna zurea da hitza

creo que tiene razón el señor consejero porque sé que es creyente en esta materia

otros representantes de los gobiernos anteriores y por eso quizás la pregunta esté mal formulada

pues yo a usted sí le reconozco una capacidad para llegar a acuerdos incluso con ese máquina recentralizador que es cristóbal montoro

que llevábamos más de diez años y que un presidente socialista y un lehendakari socialista fueron incapaces de cerrar le reconozco a usted esa capacidad incluso de llegar a acuerdos pues

de la cámara y del país y hemos conseguido llegar a dos pactos presupuestarios un pacto fiscal

cree señor consejero que podrá llegar a un acuerdo con los miembros de su partido que dirigen esas instituciones forales

no sé señor damborenea si caben dos preguntas en el mismo turno de intervención

a un acuerdo ninguna duda mire

debe continuar basándose en dos principios que a la postre son las dos caras de la misma moneda que son la neutralidad y la suficiencia financiera

de que ninguna institución resulte perjudicada por las eventuales modificaciones que hayan de incorporarse en la nueva normativa y no es fácil y por otro lado suficiencia financiera de modo o de manera que todas instituciones vascas contemos con la financiación adecuada

que tampoco es fácil pero bueno las cosas son como son no son fáciles pero desde luego existe un compromiso firme de nuestro partido de mi partido del partido nacionalista vasco y de las instituciones

las diputaciones forales y el gobierno de que esto sea así en la nueva ley de aportaciones se contemplarán además señor damborenea las disposiciones necesarias

de las competencias propias y de la financiación de los distintos niveles institucionales como

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi señora consejera a usted en relación con la no reforma educativa le gusta más hablar de forma que de fondo

de la forma la última respuesta que me dio

dijo literalmente que lo que queremos es una ley consensuada en la que todo el mundo esté a gusto una especie de spa político más que de contenido y de profundización de materia y de reformas reales yo no digo que lo del spa esté mal esto de buscar que todo el mundo esté a gusto

ver cuál es su concepto de consenso señora consejera usted nos dice que para abordar una reforma educativa para traerla a esta cámara primero requiere un consenso con agentes educativos muy bien cuál es el consenso de la señora consejera el documento base plagado de generalidades por otro lado pero ya hablaremos en otra ocasión de esto

es un documento tan consensuado que usted ha decidido sobre lo que se puede y lo que no se puede hablar

temas espinosos los deja de lado usted también ha decidido quién y sobre qué pueden hablar en esos encuentros previos usted ha decidido que se va a hablar de modelización

por lo tanto es un proceso lejos de ser consensuado profundamente teledirigido

sin haber sido contrastado o por lo menos desde el desconocimiento de aquellos que tuvieron oportunidad de decirle a usted lo que opinaban se presentaron en esa reunión había cámaras y fotógrafos

cómo había tratado ustedes y su departamento lo que habían tenido oportunidad de trasladar por lo tanto la pregunta señora consejera es en esta no reforma educativa que supuestamente usted

algo así como un despotismo ilustrado de todo para los agentes educativos pero sin los agentes educativos

porque cada vez que pone una cosa en el papel pregunta otra la vez pasada preguntó por la ley

hoy preguntaba sobre los criterios que están guiando la actual reforma educativa y me empieza a preguntar sobre el consenso y un proceso

hablar me sorprende además que usted haga esta pregunta

usted que me venga a hablar de consenso pues precisamente no sé si es una persona

a la hora de llevar un proceso un proceso participativo un proceso para buscar el consenso hay muchas formas hay muchas formas y esta es una de ellas y está avalada

lo mismo que no todos estamos de acuerdo absolutamente en todo pero desde luego este proceso se ha puesto en marcha tiene un documento tiene una participación de cuarenta personas expertas tiene un contraste y después está siguiendo un proceso realmente la mayoría de los agentes educativos mostraron satisfacción es un punto de partida es un punto de partida sobre el que trabajar

es claro de este gobierno y de este país es que trabajamos desde el acuerdo trabajamos desde el consenso trabajamos buscando esa participación ese acercamiento

cuáles son mis criterios me preguntaba yo no sé si contestarle a los criterios o a qué es lo que quiere que le conteste mis criterios yo creo que nosotros pusimos bien claro ya desde la legislatura pasada

y el objetivo partimos de un plan

acordamos con todos los agentes educativos un modelo educativo pedagógico basado en las corrientes europeas de educación un plan grabazio akatsa y después a partir de ahí construimos un currículum

que fueron participados por todos los agentes más de ochenta ochocientos aportaciones más de ochocientos aportaciones unos currículos que casualidad

la parte de equidad y la parte de inclusividad a partir de ahí un plan de mejora y a partir de ahí también pusimos en marcha dar pasos hacia una ley una ley que tuvimos un montón de reuniones con un montón de agentes que nos han dicho cuáles eran los principios sobre los que querían construir este acuerdo un acuerdo grabazio akatsa de saber exactamente cuál es

y hemos iniciado este proceso para construir la ley yo creo que tenemos el camino claro

lo relevante es si usted que es la responsable en materia educativa en este país y que gobierna y tiene una alta responsabilidad lo tiene claro y a todas luces parece que no

sino que es una pena para nuestros estudiantes y es una pena para el futuro educativo de esta país que ustedes no hagan nada que vivan en la autocomplacencia

de cuál es mi pregunta e intervención en esta tribuna esto tendrá que usted ir aceptando lo que es el parlamentarismo

es el consenso y le acabo de decir le acabo de relatar que ni tan siquiera está cumpliendo con esa palabra dada en esta cámara no está buscando el consenso porque desde el principio es un proceso teledirigido en el que usted elige los temas y usted dirige

inicialmente la pregunta señora consejera más allá de la forma es cuál es su opinión usted qué piensa de la educación en euskadi como responsable como líder como alguien que tiene que impulsar una reforma educativa qué opina de la educación concertada qué opina de su financiación futura

qué opina de que el hecho de que la mitad de los puestos de trabajo que se ofertan en euskadi exijan el conocimiento de inglés y nuestro sistema educativo no lo oferte

en su segunda intervención eskerrik asko sémper jauna

usted está totalmente equivocado porque nosotros hemos hablado con todos los agentes

el documento les hemos contado y a las personas que han participado también todos son conscientes y conocedores de todo lo que se ha ido haciendo por lo tanto no me puede decir algo que usted no sabe que usted no lo sepan no quiere decir que los demás no lo sepan

cuál es la política de este gobierno qué es lo que pensamos tenemos un programa de gobierno que está

toda una serie de iniciativas que se las hemos ido relatando en todas aquellas ocasiones que ustedes nos han cuestionado aquí por lo tanto yo creo que nuestra postura y nuestra defensa por la educación es totalmente clara lo que no tengo claro es si ustedes están de acuerdo con esa política porque creo que ya sé que no ya sé que no están de acuerdo

en el mismo madrid que es que realmente quien nos tiene en estos momentos en una situación de impás o pretende tenernos porque desde luego nosotros lo tenemos tan claro que seguimos avanzando seguimos trabajando
y seguimos dando todos los pasos que tenemos que dar eskerrik asko uriarte anderea

consejeros señorías señor consejero presento esta interpelación en nombre del grupo popular referente al futuro del observatorio turístico de euskadi observatorio que se puso en marcha a través de la sociedad pública basquetour perteneciente al departamento de industria innovación comercio y turismo del gobierno vasco

observatorio impulsado por el gobierno vasco en el año dos mil once iniciativa recogida

presentado en aquel momento en esta cámara en este plan

impulsar e implantar un observatorio turístico de euskadi que actúe como un sistema de inteligencia competitiva accesible y de referencia para el sector turístico vasco buscando su integración en la redes de conocimiento de ámbito regional estatal

el observatorio turístico de euskadi como instrumento que ayuda a dar respuesta a las necesidades informativas de análisis y estudio de la actividad

del comportamiento de los destinos y de los mercados orientado a facilitar la toma de decisiones y contando con la participación de los agentes implicados y así ha venido desarrollando su actividad este observatorio creciendo en el análisis de la información que generan y que comparten los usuarios datos internos y datos externos de otras fuentes desde el ámbito de las administraciones públicas

de los datos públicos y de tal manera que las empresas y los ciudadanos puedan hacer uso de esos datos en el desarrollo de determinados proyectos o servicios para un destino turístico la aplicación de los datos a gran escala el big data supone un elemento de ayuda en la toma de decisiones

saca a concurso la contratación de servicios de mantenimiento y evolución del observatorio turístico de euskadi y se adjudica a tecnalia en el año dos mil dieciséis y también en el año dos mil diecisiete

del observatorio turístico de euskadi obteniendo datos de valor que en base a su tratamiento y análisis ayuden a tomar decisiones y comportamientos

clasificada y convenientemente analizada para tener una visión global y completa del entorno en fitur dos mil diecisiete por ejemplo tecnalia participó en el marco del

en el grupo de trabajo de centros tecnológicos turísticos para analizar

una innovación presente en todos los sectores y con especial repercusión en el sector turístico

que produce a la hora de tomar decisiones ejecutar acciones en consecuencia con los datos que tenemos

junto con otros nueve centro tecnológicos públicos y privados que han elaborado un documento

casos de éxito que muestran el uso y la utilidad de esta tecnología en el sector y en este foro el observatorio turístico de euskadi

como un ejemplo de gestión inteligente de la información y señor consejero este es un ejemplo de cómo el observatorio se ha movido en foros de gran interés para buscar

y poder atender las necesidades reales del sector esto era el observatorio turístico de euskadi en enero del dos mil diecisiete pero señor consejero le digo era porque si hoy vamos a la web de basquetour

pinchamos en el observatorio turístico de euskadi qué nos encontramos nos encontramos esto y señor consejero cuántos meses lleva esto así cuántos meses lleva esto así

del trabajo que hacemos y de la inversión que hacemos de nuestros recursos señor consejero pero es que si vamos por otro enlace al observatorio turístico de euskadi

por ejemplo esto subtítulo de prueba prueba entradilla entradilla prueba entradilla ejemplo ejemplo entradilla

observatorio turístico de euskadi estudios y publicaciones encontramos el estudio más novedoso del dos mil trece francamente

es una pena que esta imagen se esté dando de una herramienta valiosísima herramienta que durante un periodo de tiempo ha desarrollado su trabajo de manera exitosa entendemos

señor consejero qué vamos a hacer con esto quién está manteniendo hoy dos mil dieciocho

de euskadi se ha hecho un concurso cuál va a ser el futuro de esta herramienta de trabajo señor consejero también tiene usted el observatorio turístico de euskadi en periodo de reflexión porque

que estaba en un periodo de reflexión usted cree
necesario este observatorio turístico de euskadi para el sector de euskadi del turismo eskerrik asko

consejera señorías señora lópez de ocariz

en el nombre de las cosas y no hablar de las cosas mismas lo hizo hace dos semanas a propósito del observatorio de la distribución comercial

y lo vuelve a hacer hoy a propósito del observatorio turístico de euskadi le diré

el observatorio turístico de euskadi es una iniciativa

que usted al menos menciona pero me lo pregunta por escrito pero antes ha dejado

lo mismo que se crean otros como el nanogune o el biogune con el objetivo de generar conocimiento en torno al turismo

basquetour como agencia vasca de turismo para la promoción y para

estrategia inteligente a medida que el turismo despegaba en euskadi con dos herramientas que permitían dar un soporte desde la gestión pública

del turismo en euskadi y por la otra en la generación de conocimiento en torno al turismo en dos mil diez

propone una colaboración con basquetour para la creación de un

una propuesta que yo conozco una propuesta seria una propuesta con contenido una propuesta actual

y una propuesta también ambiciosa se hablaba de inteligencia competitiva

y se hablaba de inteligencia colectiva y partía además del análisis de otros observatorios en españa y en el mundo

tres áreas de mejora y que planteaba también una estructura ambiciosa las áreas de mejora eran una armonización de las fuentes es sabido

en relación al turismo dos una visualización y la posibilidad de permitir análisis dinámico de la información y tercero la inclusión de fuentes

big data y las áreas en que organizaba esa estructura del observatorio turístico de euskadi al que usted hace referencia eran un área de estadística un área de turismo la referida

un área de estudios e investigaciones y un área de documentación en dos mil doce

planteamiento colaborativo de la creación del observatorio se crea un puesto en basquetour un puesto experto en investigación social

con el desarrollo de investigación y el desarrollo tecnológico en torno a esa investigación que desarrolla el cictourgune el cictourgune no solamente plantea

sino que empieza a desarrollar su sistema desarrolla un sistema regional de indicadores turísticos el desarrolla un monitor de precios hoteleros desarrolla

inicia el diseño de varias herramientas en torno a la creación de ese observatorio turístico de euskadi que no es como usted ha dicho un observatorio turístico de euskadi de basquetour sino un observatorio turístico de euskadi que desarrolla cictourgune con basquetour pero qué pasa en dos mil quince pues en dos mil quince hay una revisión de los cic de loscentros de investigación cooperativa y uno de los que se cierra es este cictourgune por lo tanto si se cierra cictourgune y el observatorio turístico de euskadi

el observatorio turístico de euskadi al que usted hace referencia en su interpelación ya no está lo que queda después es por decirlo así un pálido reflejo del proyecto original del observatorio turístico de euskadi que plantea

qué es lo que queda del cictourgune queda una parte de

esta pequeña parte que es la carga automática de información de fuentes estadísticas es una pequeña parte no solamente porque solamente hace referencia a algunos indicadores sino porque también no incluye las fuentes

en origen pero ante el interés del departamento por mantener en ese momento

una base de datos en torno a una serie de indicadores aunque fuera más limitada que el modelo original lo que se hace es

y contratar el mantenimiento de la información respecto de esa herramienta y eso es lo que

ha hecho efectivamente tecnalia en dos mil dieciséis y en dos mil diecisiete y recibe el nombre de observatorio turístico de euskadi

es más hay otro observatorio turístico de euskadi que es el que hace referencia una de las páginas que usted ha enseñado aquí la persona experta responsable de investigación que servía de enlace con cictourgune en basquetour también organiza dentro de basquetour

observatorio turístico de euskadi las dos cosas son cosas distintas pero las dos reciben el mismo nombre y ninguna de las dos cosas es en realidad el proyecto ambicioso y desde mi punto de vista inteligente y bien planteado de origen del cictourgune en el año dos mil diez

eso es lo que tenemos y eso es lo que queda en la difusión queda además la que hacemos desde el departamento puntualmente cada vez que damos información de los datos estadísticos

tan interesante por el mantenimiento de ese observatorio en realidad era una pequeña parte que solo incluye

y de los puertos del estado por supuesto que el departamento yo mismo

no solamente en turismo pero desde luego en turismo también mantener información del entorno porque de lo contrario la gestión pública se convierte

sin saber en qué entorno se mueve uno la inteligencia del mercado se mantiene mantenemos las operaciones estadísticas oficiales

el otro día que solo justificaba la creación del órgano estadístico del departamento ibiltur familitur frontur esas operaciones se mantienen y además

pero el observatorio como tal que no tiene que ver lo que llamamos hoy observatorio con el concepto original del observatorio turístico de euskadi en realidad no responde ni a las demandas que se le pueden hacer en el momento ni siquiera

plantea la necesidad de información también en el ámbito de la gestión turística y también obviamente para el sector

a replantear la cuestión del observatorio

efectivamente podamos llamar de tal manera como observatorio turístico de euskadi

tenía quince personas trabajando solo para el desarrollo de este observatorio turístico de euskadi

pero no me parecía opción que nos conformáramos con lo que había nos conformáramos con ese observatorio turístico de euskadi que no desarrolla todas las potencialidades que en el ámbito de la búsqueda de la creación y de la producción de datos para la gestión turística se hace necesario

sino también el de comercio partiendo de la creación del órgano estadístico para crear efectivamente un observatorio que como le digo merezca tal nombre ese es mi planteamiento por lo tanto respondiendo a su pregunta aunque ya le digo no puedo mantener un observatorio

obviamente la pretensión del departamento es mantener una inteligencia de mercado en la estructura de un observatorio que es mucho más que hacer estudios

crear una estructura de observatorio para alimentar una fuente de datos que permita al departamento y a los distintos sectores tener información
sobre el entorno en el que nos movemos muchas gracias eskerrik asko

hablo de datos objetivos nace el observatorio turístico de euskadi dos mil once la señora pilar zorrilla viceconsejera el observatorio turístico de euskadi se pone en marcha si va a youtube encuentra la rueda de prensa calcada del momento del día de septiembre del

cuándo nace en el dos mil once que estaba previsto anteriormente vale pero es que usted en los presupuestos que presenta en esta cámara en el dos mil diecisiete que era

hace una glosa de los objetivos del observatorio claro que como tenemos varios con el mismo nombre pues ahora me puede decir usted que no se refería a este sino que se refería al otro pero hay

dos años después del dos mil quince donde me dice que aquello ya se había cerrado ustedes hacen una referencia calcada al origen al dos mil once es verdad que los presupuestos del dos mil dieciocho reducen

en el conocimiento y transformación innovaciones del sector mantenemos

siguen con lo mismo entonces claro a mí me preocupa que dice usted yo le dije el otro día y le digo ahora entiendo perfectamente que usted quiera replantear

pero entenderá que yo no puedo tener no podemos tener la imagen que estamos teniendo del sector turístico en las páginas web cuando resulta que el setenta por ciento de los que quieren venir aquí entran o lo hacen mediante internet o buscan conocimiento en internet

esta imagen que es que es patética de tener esto en el taller

mire sabe qué pasa que es que creo que nosotros tenemos bueno tenemos

una riqueza enorme y variada de recursos turísticos de gastronomía de naturaleza de paisaje de cultura de patrimonio que son muchos los vascos que trabajan día a día por tener el mejor destino turístico y que las administraciones competentes

promoción turística pues tienen que estar a la altura de las circunstancias y lo que el sector demanda y tienen que preocuparse de que brille la calidad y esto no es calidad esto es chapuza

porque yo creo que si usted llega ahí y ve eso y no le gusta cierra las ventanas o sea pero ya

cerramos el acceso pero es que llevamos meses con esto aquí y usted no tendrá pecado por omisión

y además nos lo fía largo porque está replanteándose y ese replanteamiento para cuándo es ha pasado un año de legislatura

alguna base que aplicar y están replanteándose oiga año y medio le queda un año para replantear algo porque luego ya esto se cambia de estrategia

nosotros creemos que tenemos muchos deberes y muchos retos que afrontar que tenemos que progresar

implicar o darle al turismo sostenibilidad y responsabilidad ser sostenibles pero ser responsables que el crecimiento

y no atender a los nuevos deberes que los promotores turísticos tenemos y digo como administración que nos corresponde que somos competentes

pero es que esto como comprenderá esto no puede pasar si el lunes está me parece que sería

desde su departamento o sea cierren estas ventanas esto no sirve para nada más que para dar mala imagen de verdad yo creo que tenemos

y que usted es un responsable de que esto esté así

ve esto y tenía que haber cerrado la ventana al día siguiente por lo menos

viene a pedirme que mantenga porque cuando yo he parado la inercia porque quiero cambiarlo porque voy a cambiarlo porque lo estoy cambiando de hecho es cuando usted ha planteado aquí

sobre la supuesta paralización del observatorio sencillamente porque yo no me he dejado llevar por la inercia porque he mirado y visto que efectivamente había que cambiar las cosas ya le he dicho no puedo lamentablemente ejercer la misma ambición que tenía en cictourgune en dos mil diez cuando lo planteó y que efectivamente se abrió en dos mil once efectivamente

revise los datos porque como le digo no cuento ni con quince trabajadores extras para ese observatorio ni con ese presupuesto pero eso no significa que uno no deba ser ambicioso y que cuando

trate de hacer con lo que tiene todo lo que pueda para que efectivamente tengamos algo que

el nombre de observatorio y efectivamente tengo un planteamiento de hecho en el caso concreto de las páginas web ya llevamos trabajando desde enero en el cambio de esa página web no se preocupe

porque no tiene fotocopia de ella que la página de tecnalia con los datos

y de puertos del estado se abrió el año pasado porque tampoco estaba accesible ni para los usuarios ni para usted si quería comprobar esa página le decía que efectivamente tengo planteamiento ya le he dicho antes

no es intención del departamento ni mía propia

no podemos conformarnos con lo que hay es necesario reorganizar esta labor en algo que efectivamente pueda llamarse observatorio para ello

el primer paso imprescindible es la creación del órgano estadístico del departamento que no tenemos el decreto está hecho están pasados los distintos informes y nos queda solamente uno que es de la oficina

de estadística el segundo paso es diagnosticar la situación cuáles son las posibilidades

pertinentes cómo priorizar recursos minimizar costes

y en definitiva establecer objetivos precisos y coherentes de estudio e información y en tercer lugar integrar en lo posible las distintas áreas del departamento tanto la optimización de recursos como la característica no compartimentalización de la información

imponen a mi juicio la necesaria transversalidad también en el planteamiento de ese observatorio del departamento independientemente del margen de acción que pueda tener

transversalidad al abordar esta labor lejos de visiones esquemáticas segmentadas y viejas muy viejas señora lópez de ocariz

al abordar la información en este siglo es preciso aplicar inteligencia competitiva

colectiva y eso es lo que yo pretendo desarrollar en torno a un

del departamento que efectivamente cumpla con los objetivos no solamente de producción de la información pertinente sino también de difusión

llegue al sector para que el sector pueda utilizarla en

estrategias eso es lo que a mí juicio no se cumple de manera todo lo adecuada que debería ser en el momento actual

porque lo mismo que me ocurrió con ikusmer y se lo conté hace dos semanas pasaba con este mantenimiento muy parcial de una parte muy pequeña del trabajo de cictourgune por parte de tecnalia

en el que yo entré y es cuando yo he podido actuar cuando he parado cosas para no dejarnos llevar por la inercia y asentar

es cuando he podido hacerlo y es el momento en el que usted ha hecho preguntas eskerrik asko

consejera quisiéramos hoy interpelarles sobre el control

por parte de su departamento y por parte del gobierno contra las llamadas horas extras contra las horas extraordinarias en las empresas como usted sabe la

de la de nuestro entorno y en esa realidad nos encontramos con una cuestión que para mi grupo parlamentario no es menor que es la utilización abusiva por parte de las empresas de horas extraordinarias como herramienta para abaratar costes en mano

generando graves prejuicios no solo a las y los trabajadores que también sino al conjunto de la sociedad

son más de seis millónes de horas extra por año las que se hacen seis millónes de horas extra que conocemos según los informes e investigaciones pero que no son

que no son detectadas pero que se hacen será además una tendencia al alza en la realización

en el año dos mil dieciséis respecto al año anterior en concreto un treinta y seis por ciento de aumento es decir pensamos que vamos en la dirección contraria a la que deberíamos ir teniendo en cuenta que tenemos una tasa de desempleo declarado por encima del diez por ciento

son ilegales no entran dentro de los supuestos recogidos en el estatuto de los trabajadores por lo tanto estamos también

de la legalidad un incumplimiento de la legalidad que se desarrolla de manera continua e intencionada de manera continua e intencionada para ahorrar costes es decir estamos ante

para obtener beneficio propio generando graves perjuicios a la sociedad

en otro ámbito que no fuera el laboral seguramente se hubiera actuado con mucha más

permisividad enorme con la cuestión de las horas extras y no me refiero solo a su gobierno y a su departamento que también una permisividad en general en nuestra opinión se deben hacer los máximos esfuerzos para que como mínimo se cumpla la ley en relación con las horas extras el objetivo

no puede ser otro que cero permisibilidad con las horas extras ilegales pero también una lucha específica contra

realizando horas extras las horas extras en primer lugar

son el alargamiento de las jornadas laborales lo cual afecta a su propia salud física y psíquica son horas extras que en la mayoría de los casos son obligadas y digo obligadas aunque legalmente son voluntarias y muchas y muchos trabajadores las hacemos diciendo que las hacemos voluntariamente en realidad se hacen por obligación

pues el trabajador dice que sí que está dispuesto a hacerlas pero la realidad es que acepta por diferentes obligaciones

por necesidad económica ante los salarios insuficientes o simplemente por responsabilidad porque muchas y muchos trabajadores que si no hacemos esas horas se queda el trabajo sin hacer con consecuencias negativas para la propia empresa y para terceros como clientes etcétera y por lo tanto en esos casos también son horas que en realidad no son voluntarias en segundo lugar las horas extraordinarias

para una sociedad en la que los cuidados y la sostenibilidad de vidas dignas tengan un lugar relevante

extienden jornadas laborales y restan tiempo para el cuidado familiar las personas que hacen horas extras tienen mayores dificultades para dedicar el tiempo suficiente y dar respuesta a las necesidades de la familia son un obstáculo para la corresponsabilidad mujeres

y estado deberían compartir la responsabilidad que supone cuidar a las personas dependientes que viven en nuestra sociedad niñas niños adolescentes personas adultas personas con diversidad funcional o dependientes temporalmente por enfermedad accidente etcétera

es aquella entre otras muchas cosas que promueve horarios que permitan dedicar tiempo a la vida y cuidados familiares por eso cuando una empresa establece horas extras está atacando a la igualdad entre mujeres y hombres está atacando a la conciliación a la corresponsabilidad y a una sociedad más respetuosa con la sostenibilidad de la vida de todas y todos las horas extra son un obstáculo para la igualdad y mujeres y para reducir la brecha salarial en el mercado laboral debido a la división sexual del trabajo son generalmente hombres quienes suelen asumir horas extraordinarias por lo que restan tiempo para el cuidado de la familia

cuando las horas extras son utilizadas para que trabajadoras y trabajadores demuestren su disponibilidad y compromiso con la empresa y su carrera profesional las mujeres que se niegan son estigmatizadas o no tenidas en cuenta para hacer carrera en la empresa son causa

las horas extras tienen consecuencias negativas para el conjunto de la clase trabajadora porque su realización impide la creación de miles de puestos de trabajo cada año

al menos seis millónes de puestos de trabajo al año debido a las horas extras existentes a las empresas les sale más barato alargar las jornadas de quienes ya están en plantilla

generando una situación inaceptable donde miles de trabajadoras y trabajadores se ven obligados a trabajar por encima de su jornada ordinaria con consecuencias como he dicho para su salud mientras que

que buscan esta es una contradicción que el gobierno tiene obligación de resolver si se quiere tener una sociedad más justa y equitativa socialmente en nuestra opinión

usted señora san josé el gobierno tiene que ser garante del reparto del empleo una cuestión de la que se habla muy poco desgraciadamente en cuarto lugar

no cotizan esto además de una ilegalidad supone un autentico fraude masivo a la seguridad social que tiene como consecuencia la merma de los recursos destinados

una merma para la caja de las pensiones en estos momentos se está dando una importante movilización impulsada por pensionistas y jubilados en defensa de nuestras

estamos permitiendo un nuevo elemento más de merma de las pensiones públicas si por el contrario el gobierno

la guerra sin cuartel a este tipo de prácticas conseguiremos también aumentos los ingresos pensiones son en definitiva varias razones no todas pero varias razones en nuestra opinión de mucho peso para que el gobierno y el departamento de trabajo en particular se pongan las pilas y se conjuren para conseguir un auténtico cambio en la racionalización de las jornadas laborales

de horas extras la realidad en estos momentos es que las horas extraordinarias están totalmente normalizadas en nuestra comunidad autónoma

podrían tener un papel fundamental para acabar con esta situación si se lo propusieran por ello le hacemos esta interpelación le pregunto directamente señora consejera

están dispuestos a iniciar una guerra política contra una práctica que perjudica a la clase trabajadora a los y las pensionistas y al conjunto de la sociedad y que solo beneficia a unos pocos nuestra pregunta nuestra interpelación es si están dispuestos a iniciar esta guerra política o por el contrario si les parece suficiente lo que se está haciendo

la realización de horas extras que como le digo están muy normalizadas en nuestra sociedad lo que se está haciendo hasta el momento en nuestra opinión ya le digo es del todo insuficiente

se actúa ante denuncias sí pero creemos que hace falta una actuación mucho más decidida con un impulso político creemos además que estamos en el mejor momento recogiendo sus palabras para hacerlo ustedes han sacado

que en estos momentos inspección de trabajo cuenta con la más amplia plantilla que ha habido en euskadi en toda nuestra historia por lo tanto si esto es así

eguerdi on guztioi señor hernández plantea usted un asunto de suma importancia que afecta a una gran parte de trabajadores y trabajadoras de nuestro país

y en las mujeres créame señoría que comparto su preocupación por este asunto y espero que podamos coincidir también en las propuestas para resolverlo

usted y yo en que la explicación al aumento de las horas extras trabajadas el descontrol de las mismas e incluso a la existencia de horas trabajadas no computadas y por lo tanto no remuneradas está en la desregulación del mercado de trabajo que han provocado las reformas laborales de los sucesivos gobiernos del partido popular como bien sabe usted el real decreto ley tres barra dos mil doce de diez de febrero de reforma del mercado de trabajo

queda a partir de ese momento en manos de los empresarios una gran capacidad para fijar las condiciones laborales entre ellas la fijación del tiempo de trabajo la realidad es que el contrato a tiempo parcial pensado entre otras cosas para la generación

a trabajadores y trabajadoras de conciliar la vida laboral y familiar se ha convertido en una oportunidad para que algunos empresarios cometan fraude y conviertan de hecho un contrato a tiempo parcial en un puesto de trabajo a tiempo completo encubierto fue otro real decreto ley

para incrementar las horas complementarias tanto pactadas como voluntarias todo ello unido a la discrecionalidad del empresario para la concreción de los tiempos

ha provocado que el contrato a tiempo parcial pierda su sentido

pasa a ser una práctica extendida con una cantidad de horas extras no controladas y en casos no remuneradas la consecuencia para trabajadores y trabajadoras degradan las condiciones laborales y por otra parte se defrauda a la seguridad social al dejar de ingresarse las cotizaciones correspondientes usted lo ha dicho en su diagnóstico para controlar esta situación y para reparar los daños que se causan a los derechos laborales

que posibilite el control de las horas extras efectuadas por cada persona trabajadora esta obligación no está claramente recogida en la legislación laboral el estatuto de los trabajadores en su artículo treinta y cinco que se refiere a las horas extras

pero el artículo treinta y cuatro no la recoge para la jornada esta situación se ha complicado más con la reciente sentencia del tribunal supremo que absuelve a bankia de llevar el control

apoyándose precisamente en el artículo treinta y cinco del estatuto de los trabajadores al hilo de esta situación se deduce inmediatamente la necesidad de modificar la ley básica que es el estatuto de los trabajadores adoptar

de todas y todos los trabajadores independientemente de la modalidad contractual

otra puede ser la regulación del contrato a tiempo parcial para que este se atenga a su verdadero carácter y no se permita una utilización fraudulenta también puede adoptarse la medida de revisar las sanciones por incumplimientos de las obligaciones

que el ámbito en el que se pueden alcanzar estos propósitos no es el de la comunidad autónoma los cambios legislativos han de efectuarse en el congreso de los diputados y algunos

la certeza de que comparto su preocupación por este asunto y la voluntad para procurar esos cambios normativos y esta preocupación

por mi parte considero muy positivas algunas iniciativas que se están tomando en el congreso como usted bien sabe el partido socialista ha impulsado dos proposiciones no de ley

y que se referían a al asunto que usted ha traído hoy a esta cámara

a realizar los cambios normativos y a impulsar las medidas que lograran el control efectivo de la jornada laboral de todos y todas las trabajadoras y la reforma de los contratos a tiempo parcial entre otras de todas formas dado el carácter

las propuestas de la mayoría parlamentaria no están obteniendo el éxito deseado por eso también

una proposición de ley para modificar el artículo treinta y cuatro

de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores la obligación de registrar diariamente incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador esta proposición de ley ha sido admitida a trámite y en estos momentos se encuentra en periodo de enmiendas

esta sea aprobada y de esa manera podamos contar en todo el estado con una efectiva herramienta para poder combatir el fraude en los contratos y la realización no controlada de horas extras hasta ahora me he referido a lo que considero fundamental para lograr el objetivo que

pero ahora voy a detallar las acciones que dentro de nuestras competencias estamos poniendo en práctica desde el departamento de trabajo y justicia para incidir en la cuestión que estamos tratando en la comunidad autónoma tenemos dos instrumentos esenciales uno es la inspección de trabajo y seguridad social y la otra es la negociación colectiva en la respuesta que

de la inspección que depende de nuestro departamento y una de las materias en las que se despliega su actividad la inspección de trabajo es la de las relaciones laborales pues bien de ellas las dirigidas especialmente al control del tiempo de trabajo han sido durante

quinientos setenta y dos casi un ocho por ciento más que en dos mil dieciséis por otra parte es usted conocedor de nuestro propósito de realizar un esfuerzo añadido por revisar los contratos temporales y a tiempo parcial y los resultados en esta campaña no puede ser más alentadores de los quince mil contratos revisados durante dos mil diecisiete

o bien eran contratos temporales y han sido transformados en indefinidos o bien eran contratos a tiempo parcial y han visto incrementada su jornada como consecuencia de la actuación inspectora espero que participe conmigo en lo positivo de estos datos y además puedo asegurarle

va a ser constante esta línea va a ser constante a lo largo de toda la legislatura

ha sido potenciada desde el departamento y lo va a seguir siendo

prioritaria a todas las denuncias de organizaciones sindicales o de trabajadores y trabajadoras en estos aspectos de la relación laboral la otra vía de actuación es impulsar la negociación colectiva ya me ha oído decir en varias ocasiones que las reformas laborales de los

del partido popular están mediatizando la negociación colectiva a nivel general pero pienso que hay un margen para potenciarla la negociación colectiva depende básicamente de la voluntad de las partes de los empresarios y de los representantes de los trabajadores y el convenio colectivo tiene que ser

en el que se deben de recoger todas las circunstancias que afectan a su vida laboral no solamente condiciones salariales dispositivo perfecto para que mientras no se apruebe esta proposición de ley que he citado anteriormente pueda registrarse y concretarse la jornada laboral si así lo acuerdan las partes para finalizar

que exige el concurso y la suma de actuaciones a diferentes niveles tengo la seguridad que desde el departamento de trabajo y justicia vamos a colaborar

para acabar con el problema del fraude laboral y las horas extras excesivas

no vengo a pedirles a ustedes que hagan cosas que no están en su ámbito

de los diputados están haciendo las iniciativas a la que usted ha hecho

de las jornadas pero a nosotros lo que nos interesa y entiendo a que usted le debería interesar

que tiene en estos momentos yo me alegro de que haya reconocido

muy importante y un problema real porque lo cierto es que como decía en mi anterior intervención es una absoluta ilegalidad que se comete de manera diaria en multitud de empresas en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto yo creo que la herramienta a la que usted ha hecho referencia que es la inspección de trabajo es la que tiene que tener en nuestra comunidad

fundamental y por eso yo le interpelaba si están ustedes dispuestos a declararle la guerra a este tipo de prácticas porque la negociación colectiva efectivamente es una herramienta importante

en estos momentos sabemos las dificultades que tiene la negociación colectiva por la posición que mantiene la patronal ante las reformas laborales que usted ha citado que la colocan en una situación en una posición de forma que le permiten estar cómoda y por lo tanto

además de esa situación de paralización de las relaciones laborales los convenios colectivos incluso aunque recojan

de la no realización de horas extras o de la limitación de las mismas el problema que nos encontramos es el incumplimiento yo me estoy refiriendo al incumplimiento entonces si yo antes me refería a horas extras ilegales las reguladas por negociación colectiva

que recogen esta cuestión pero en la práctica diaria de las empresas se hacen y yo creo que inspección de trabajo puede hacer una mayor labor con respecto a las horas extras

tengo los datos en la cabeza yo no he venido a cuestionarle sobre lo que han hecho este año o

dos mil dieciséis sino a interpelarle de cara a futuro sobre

no es suficiente no es suficiente yo no digo que esté mal pero no es suficiente a la vista de que

de horas extras en las empresas a nosotros nos parece muy bien que ustedes hagan una campaña para revisar los contratos de trabajo sabemos que han detectado un montón de irregularidades lo sabían ustedes que las iban a detectar antes de lanzar la campaña porque el contrato

está en fraude de ley en el noventa y seis por ciento de los casos eso lo sabe cualquier sindicalista lo que pasa que

hasta que no hay un despido un falso despido porque efectivamente no deberían de ser contratos de obra porque tienen una causalidad y no se hacen para eso

pero detectar esos tipos de contratos no va a ser la herramienta fundamental para acabar con las horas extras a nosotros nos parece bien que ustedes hagan esa campaña pero yo hoy venía a interpelarle

deberían hacer también una campaña para perseguir las horas extraordinarias porque no se persiguen no se persiguen abiertamente mire yo le voy a poner un ejemplo

de la legislación hay un sector concreto que yo conozco muy bien que es el de transporte efectivamente no hay obligación de recoger las horas extras

pero los camioneros cuentan con una ventaja en este sentido están obligados por leyes de tráfico en este caso a llevar un tacógrafo un tacógrafo que registra las horas que trabajan eso es una herramienta para perseguir

por ejemplo en este sector y esa es una herramienta que se debería utilizar y que nunca se ha utilizado y que se ha reclamado también siempre por lo tanto

claro que hay que echar para atrás la reforma laboral la del partido popular y no voy a decir que lamento decirlo porque es lo que pienso y también la del partido socialista que también fue regresiva y abrió las puertas

pensamos que también que su departamento tiene posibilidades para luchar contra esta cuestión concreta que es una anormalidad y una ilegalidad con graves consecuencias

señor hernández como le decía antes la mejor solución está en los cambios normativos a los que me he referido

que hay que apelar a la responsabilidad de todos los partidos políticos que se han expresado en contra de esa reforma laboral para que se pongan de acuerdo para que la proposición de ley en trámite en fase parlamentaria salga aprobada con éxito esté seguro señoría

por nuestra parte vamos a seguir repitiendo las campañas planificadas de la inspección de trabajo y seguridad social detectar las irregularidades y corregirlas nuestro empeño no va a cejar en intentar revisar todas las cuestiones que entendemos

puede haber fraude y corregirlas somos también conscientes que hay colectivos más vulnerables

la denuncia vamos a decir ordinaria bien directamente por el propio trabajador o las organizaciones sindicales a veces tiene dificultades para realizarse

laboral que facilita esa denuncia anónima que posteriormente podrá ser investigada por la inspección de trabajo también conocemos que hay sectores productivos y usted ha señalado alguno en los que por especiales características o por las características de la subcontratación pueden acarrear más situaciones anómalas como le he dicho a la señora sánchez

las prioridades en las campañas de la inspección de trabajo se van a centrar en sectores en los que vemos vulneración como los sectores feminizados

superar la brecha salarial y aflorar las irregularidades de los contratos a tiempo parcial cuya incidencia sobre las horas extras

incidencia le reitero nuestro empeño por atajar cualquier situación que contravengan las leyes y vamos a seguir actuando de manera planificada

alcanzando con todos los medios que tenemos y que disponemos llegar al mayor número de empresas de nuestra comunidad estamos superando

dos mil siete pero la recuperación económica no puede ser a costa de devaluar las condiciones laborales

económico debe venir con mejora de salarios con mejores y más estables contratos y que desaparezca ya la brecha salarial para conseguir estos objetivos es imprescindible la negociación colectiva y en el departamento de trabajo y justicia estamos

entre las organizaciones más representativas y confebask dé sus frutos como le decía antes el gobierno no pacta los convenios pero

a que las partes acuerden a que cada día haya más trabajadores y trabajadoras respaldados por convenios en los que se establezcan y se dejen todas claras estas cuestiones que décimos que como están en el aire

trae problemas nuestro deseo es que las personas que trabajen en pymes

puedan beneficiarse de las garantías que ofrece un convenio para ello

por otra parte el tiempo de trabajo y las horas extraordinarias inciden en otra vertiente del problema que ya lo hemos comentado que es la conciliación de la vida laboral y familiar dentro de las competencias del departamento de trabajo y justicia se encuentran las referentes a la

por ello vamos a marcarnos como un objetivo prioritario de ella incentivar que los convenios colectivos se concreten los horarios y se registren los mismos